egun on volvemos hoy con uno de esos temas de comer que

además del número total también es preocupante la distribución del colectivo que cuenta

eta lana bilatzeko zailtasun handiak dituzten pertsonentzat aunque tengas cincuenta años de experiencia si no tienes un certificado profesional que lo acredite

tienes que vivir ahora ya es tarde no preveía esta situación y menos con veinticuatro años cotizados no se preocupe usted ya le llamaremos

siempre surge algo no te dicen que es por la edad pero siempre te sacan algo he echado muchos currículum y llamado a muchos sitios pero nada

todo para mí significaría autoestima y saberte útil una situación crítica pero vamos a pensar que se puede salir amaia

sé que me dirán como en otras ocasiones que esta realidad les preocupa y les ocupa y tampoco lo pongo en duda

no existe y sobre lo que no existe no se actúa y la realidad es que cuando se meten en un gran saco realidades tan diferentes y necesidades tan diferentes perdemos eficacia la realidad es que cuando un asunto es realmente prioritario

es el caso del esfuerzo que este gobierno plantea para la incorporación de las personas jóvenes y que nosotros compartimos pero que no aparece recogido para el colectivo de personas

esfuerzos no estamos acertando con las actuaciones para las personas paradas de larga duración

con ese grupo de personas en situación más vulnerable en conjunto sea la más indicada

y no siempre se ajustan a la realidad y a las necesidades de las personas paradas de larga duración

por qué las contrataciones de los planes comarcales duran seis meses y no ocho alguien me puede explicar por qué no se podría flexibilizar esa medida y pensar en otras opciones también son muy diferentes las

tienen una mujer que ha sido víctima de violencia machista

parada son muy diferentes las necesidades de formación de una persona con discapacidad

creemos que hay que responder a necesidades específicas de manera diferenciada

arazoak dituzte pertsonei eskaini diezaieketen programak eta aukerak betikoak dira y desde luego la solución no va a venir de programas tan lamentables como el prepara por mucho que los maquillemos aquí eh bildu considera que estamos ante una situación excepcional prioritaria diferenciada

que requiere como señalan los y las expertas en este ámbito una atención excepcional una solución a la carta jauzi kuantitatibo eta kualitatibo bat eman beharrean gaude

un plan diseñado ad doc un plan de choque que garantice

a estas personas que les ofrezca medidas concretas de formación

que estén ajustadas con lo que está demandando el mercado y las oportunidades que se presentan un plan que haga importantes esfuerzos para la coordinación interinstitucional

un plan que contemple incentivos masivos para la contratación que contemple

que reconozca y certifique la experiencia laboral y que fomente los cambios necesarios en la rgi

tamaina berdineko neurriak ante situaciones excepcionales medidas excepcionales como se hace en otros muchos ámbitos medidas de choque y recursos

no vale y es también una pena porque esta moción consideramos que venía en un muy buen momento cuando todavía no se ha presentado la estrategia cuando están los presupuestos por cerrar

estábamos a tiempo y todavía estamos a tiempo

paradas de larga duración se han olvidado de nosotras decía una de esas personas que he mencionado antes nos han dejado solos

para rescatar a las personas eso es lo que necesitamos y como todavía estamos a tiempo porque estamos a tiempo quizá hoy no vayamos a llegar a ese acuerdo amplio pero sí le pediría aprovechando que

que las cosas que se plantean hoy ya que van a seguramente contar con un apoyo muy grande de esta cámara sean tenidas en consideración y que no se olviden ustedes que no metan en ese gran saco a las personas paradas de larga duración porque tienen una problemática muy específica es un reto que tenemos como país y a eso hay que responder mila esker

egun on desde nuestro grupo parlamentario elkarrekin podemos la verdad es que recibíamos

de eh bildu por tratarse de una iniciativa que en sus objetivos al menos así parece

aportar mejoras interesantes a la hora de hacer políticas destinadas a los parados de larga duración y por lo tanto es un tema que nuestro grupo considera que tenemos que tener una especial sensibilidad el conjunto de grupos de la cámara

de especial incertidumbre en su vida cotidiana y de especial incertidumbre

y trabajadores con especiales dificultades para acceder a puestos de trabajo y poder así desarrollar sus proyectos de vida para poder así

condiciones dignas por eso nosotros abordamos la iniciativa analizando lo que en ella se proponía y encontrándonos con que bueno coincidimos había un amplio acuerdo en lo que

proponente e hicimos una enmienda a la totalidad no tanto con espíritu de enmendar a la totalidad

de estar en el debate reforzar los criterios que se planteaban e incluir algunos elementos que a nosotros nos parecían interesantes y que

mejorar la iniciativa pensábamos además que se trataba de una iniciativa que por sus características podría haber llegado a un amplio acuerdo en esta cámara porque pensábamos que no era

sino a incidir en posibles mejoras porque toda política

es mejorable y por lo tanto lamentamos que no haya habido finalmente un acuerdo nuestra disposición era la de que hubiera un acuerdo y así se lo transmití yo al grupo proponente

algunas cuestiones que planteábamos en el tintero en aras de que hubiera ese acuerdo que finalmente no ha sido y que en nuestra opinión solo puede responder

al gobierno por entender que si se aprobaba

pudiera ser entendido por la sociedad como que se le estaba haciendo una crítica dura al gobierno en su gestión de las políticas respecto a los desempleados de larga duración y por lo tanto que se le estaba enmendando la mayor al gobierno

no era así nosotros coincidimos y voy a describir algunos elementos de la iniciativa original que están lógicamente en la transacción

en primer lugar la cuestión de la atención individualizada que seguramente se va a decir aquí que ya existe hoy en día y que nosotros vamos a firmar que no existe como tal no hay una atención realmente

para este colectivo de trabajadoras y trabajadores una atención individualizada para nosotros tiene que ser el acompañamiento total a estas personas en todo un proceso que solo finaliza

están trabajando en condiciones dignas no se trata solo de ofrecerles cursos de formación no se trata solo de ofrecerles orientación se trata de hacer un acompañamiento real hasta conseguir el objetivo de su inclusión en el mercado laboral y de que tengan trabajo

individualizada necesita un segundo elemento que estaba en la iniciativa y que nosotros consideramos muy importante que es la coordinación de los diferentes agentes socioeconómicos

individualizada si lo hace solo y no cuenta con elementos de coordinación entre los agentes socioeconómicos un tercer elemento

a nosotros nos parece muy importante yo sé que algunos grupos de esta cámara no están tan de acuerdo con esta cuestión o al menos tienen menos recorrido en esta cuestión nosotros creemos que hay que explorar al máximo en las contrataciones públicas los elementos para garantizar contratación de desempleados de larga duración porque estamos hablando

dentro de los desempleados y por lo tanto desde lo público tenemos una obligación porque tenemos

para hacer que haya cláusulas sociales que permitan la máxima contratación de las personas que más lo necesitan en este caso de los desempleados y desempleadas de larga duración

de desempleo y que no es una cuestión que vaya aparte de los procesos destinados a que encuentren puestos de trabajo yo ya he defendido aquí que con una mejor

de las desempleadas se mejora también su capacidad para encontrar trabajo y por eso ahí hay algunos elementos en la iniciativa que nosotros compartimos

y luego finalmente desde luego el del asesoramiento que tiene que ser un asesoramiento mucho mejor que el que en este momento se está dando por parte de lanbide que va

no por la falta de empeño de las trabajadoras y trabajadores de lanbide que nos consta que es muy grande sino por la falta de capacidad de medios y por los problemas que ha tenido lanbide

bien nuestro grupo añadía tres elementos que pensábamos que enriquecían la iniciativa que voy a describir brevemente

y que creo que al menos en la retórica

no se trata solo de atender a las necesidades del mercado no se trata de adecuar

a las necesidades del mercado como si las trabajadoras y los trabajadores solo fuesemos herramientas a las que hay que adecuar en base a las necesidades de los empresarios

que haya que hacerlo pero hay que adecuarse también a las propias necesidades de los trabajadores y las trabajadoras que también tienen anhelos o esperanzas concretas de qué tipos de trabajo encontrar y creemos que eso también hay que tenerlo en cuenta en esta cuestión una segunda que tenía que ver ha explicado

sobre la certificación de conocimientos una de las características de muchas de estas desempleadas y desempleados de larga duración es que tienen

pero que en estos momentos se encuentran en esa situación de desempleo y esa experiencia laboral que tienen no se refleja en muchos casos en certificaciones que en cambio las empresas hoy en día sí requieren por poner un ejemplo concreto para que se entienda

hace años no se requería ninguna certificación ningún título

y hay personas de cuarenta y cinco o de cincuenta y cinco años que manejan la carretilla perfectamente porque han trabajado durante veinte o treinta años con ella pero no tienen esa certificación

que alguien que no haya trabajado todavía y se haya sacado un curso de veinte o de cien horas

que tiene que haber elementos para adaptar esto y para permitir que esos conocimientos sean también certificados y finalmente nosotros incluíamos algunos elementos

en cuanto a instar al gobierno central no tanto por que esperemos que el gobierno del señor rajoy vaya a hacer caso a esas instancias

hubiese salido un acuerdo respecto a desempleados de larga duración nos parece interesante también incluir este elemento como denuncia de lo que ya dije en esta cámara hace dos semanas que es un recorte en las prestaciones a partir del sexto mes un recorte del diez por ciento

brutal para las condiciones de vida concretas de esas trabajadoras y trabajadores por lo tanto nosotros estamos de acuerdo con la iniciativa que se proponía

enriquecer con algunos elementos que nos parecían interesantes

que haya habido ese vértigo por parte de los grupos que apoyan al gobierno y que no hayan sido capaces

es que el gobierno siga haciendo lo que está haciendo y creo que eso no es una iniciativa de impulso al gobierno y que por lo tanto no hubiera servido de nada lamentamos

ni tan siquiera de mínimos para una cuestión tan importante

pues mire no tenía intención de iniciar mi intervención echándoles la bronca pero me veo en la obligación de hacerlo porque aquí se ha reprochado incluso en la última fase en la intervención del señor hernández

acuerdo y yo les preguntaría a la señora kortajarena y al señor hernández en qué momento me han llamado ustedes para saber si yo estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con ustedes

se han preocupado en saber si yo verdaderamente tenía voluntad para llegar a un acuerdo qué pensaba qué análisis hacía de la iniciativa que ustedes han presentado

porque es mentira porque es mentira y se lo tengo que reprochar lo siento mucho

tengan todavía en la cabeza que el gobierno únicamente son estos señores

muy importante y que les agradecería que cuando ustedes tratan estos temas por favor se dirijan también a nosotros

nosotros hubiéramos hecho un esfuerzo por convencer a todo el mundo para llegar a un acuerdo y no lo han hecho y me da mucha pena porque creo que hemos perdido una gran oportunidad

como el que nos ocupa por tanto después de esta

que para el grupo parlamentario socialista evidentemente existe una gran preocupación con esta cuestión estamos muy preocupados por supuesto que sí

ni el análisis de la objetividad de unos datos que dicen lo que dicen y que dicen que euskadi es la comunidad autónoma que tiene

de larga duración y que en el último año es la comunidad autónoma que en menor porcentaje ha descendido en ese número y lo reconocemos

y asumimos nuestra responsabilidad como gobierno independientemente de que no sea una cartera socialista

porque el gobierno no es un partido o es otro partido es un gobierno por tanto dentro de nuestro compromiso dentro de nuestra responsabilidad le puedo asegurar que sé de buena de tinta que este gobierno también está comprometido

a mejorar las herramientas y a poner encima de la mesa todas aquellas cuestiones necesarias para atajar este problema porque

nosotros como grupo parlamentario socialista y como parte de este gobierno también tenemos muy claro que este es un tema tremendamente sensible porque detrás de cada parado de larga duración hay un gran problema hay un drama personal y mire yo aquí no les voy a traer en ningún momento ni cosas que han salido en el periódico

de mi caso concreto porque lo he vivido en casa y sé la crudeza y la dureza que supone tener en casa un parado de larga duración

quiero que sepan que cuando menos este parlamentario está tremendamente comprometido con esa cuestión porque lo ha sufrido por tanto voy al principio me duele especialmente que hoy haya pasado eso en esta cuestión concreta creo que tenemos un reto mientras exista un parado de larga duración en euskadi un solo parado creo que este gobierno tiene un reto

hay auténticos dramas hay frustración hay falta de esperanza hay un futuro incierto hay puertas que se cierran hay excusas vagas que te la pegan en los morros por tener una determinada

pero en este momento yo quiero hacer un alegato a todas esas personas

instrumento de las diputaciones forales en las lanzaderas de empleo están trabajando y dejándose la piel por conseguir alternativas para esas personas

y que hacen una terapia grupal en muchas ocasiones que es tremendamente válida y que les hacen ver que todavía siguen teniendo futuro y que es posible que consigan trabajo y que a través de la formación trabajando su autoestima les hacen ver

tener un empleo a su edad y en sus circunstancias y me parece tremendamente admirable porque los que hemos empezado haciendo política desde abajo y nos ha tocado estar

y hemos tenido que tener frente a frente y mirando a los ojos a ciudadanos que nos traían dramas de este estilo

y es muy duro para esas personas tener que afrontar y tener que escuchar dramas como los que cada día les ponen encima de la mesa por tanto hoy aquí quiero poner en valor la labor

a esas personas por tanto yo creo que en la apertura de ese

hay instrumentos hay herramientas hay un programa marco de empleo habrá programas anuales habrá estrategias de empleo que las pondrá en marcha este gobierno

que evidentemente tendrán su margen de mejora por supuesto que sí

todo tiene un margen de mejora en esta vida todo y esto indudablemente también y mientras sigamos teniendo

para atajar ese problema y qué quieren que le diga pues sí pues puedo estar muy de acuerdo en muchas de las cuestiones que ustedes hoy han puesto encima de la mesa a través de esa moción

de empleo que tiene ya en marcha este gobierno estén exentos de la mayoría de las cosas que ustedes han puesto en esa moción porque todas se están haciendo y también creo que hay que ser justas podrán tener mejor resultado o peor resultado lo analizaremos

los mejorará se analizará para eso estamos margen de mejora pero creo que todos los instrumentos y todas las cuestiones que se han puesto en esa moción están ya incorporadas

por tanto creo que de lo que se trata no es de decir que hay que hacerlas sino entre todos procurar mejorarlas para que sean lo más eficientes posibles claves creo que son varias la atención individualizada pero como le decía tan importante como la atención

que ayuda mucho que ayuda mucho en motivación en autoestima es un trabajo que creo que también viene a completar ese trabajo individualizado

han sufrido o están sufriendo el paro se lo dice un parlamentario que pertenece a una comarca que lo ha sufrido especialmente y creo que es muy importante el trabajo de las agencias de desarrollo comarcal los planos de empleo adaptados a colectivos concretos en este caso

las contrataciones públicas que me consta que en muchísimos ayuntamientos ya se están haciendo no solo por parte del gobierno sino también por parte de gobiernos municipales de gobiernos

la formación fundamental el reciclaje de esos trabajadores y de esas trabajadoras en fin creo que todo eso está ya está plasmado en programas se están poniendo en práctica y evidentemente habrá margen de mejora se trata

de devolver la autoestima de devolver la dignidad porque el trabajo

mucho y estoy convencido que si existe voluntad por parte de todos por qué me hace eso señor bollain

tanto o más como yo pero yo le puedo decir que el trabajo dignifica mucho por eso lo decía no sé porque me tiene que hacer usted esos tan elocuentes como decía se trata de devolverles la dignidad de devolverles el horizonte y de devolverles un futuro que creo que les pertenece porque a esta sociedad han aportado mucho desde su trabajo

corresponderles de la manera debida por tanto espero y deseo que en lo sucesivo seamos capaces entre todos con sinceridad
y sin sesgos de poder llegar a un acuerdo porque creo que será un acuerdo muy positivo para toda esa gente eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak arregi anderea zurea da hitza

al empezar su exposición de hoy y sí estamos de acuerdo y no vamos a poner en duda gaiaz arduratuta zaudetela gu gauden

langabezi tasa bajatzea horretarako

mensuales trimestrales semestrales anuales de los distintos años en los que la crisis ha golpeado con mayor crudeza y su comparación y evolución tenemos claros todos y todas cuáles son los colectivos que han sido más azotados por la misma y por lo que requieren medidas específicas

para no cronificarse en dicha situación estoy segura que compartimos que aunque no estén todos algunos de estos colectivos y

que merecen especial atención debido a su especial situación de vulnerabilidad son el de mujeres los y las jóvenes parados las personas paradas de más edad las de larga duración siendo este último colectivo el que nos ocupa en el debate de hoy y también estoy convencida que cada una de las personas

y además pudiendo estar algunas de ellas en más de uno porque pongámonos una mujer mayor de cuarenta y cinco años que ha sido objeto de violencia de género

todas y cada una de estas personas con independencia del colectivo al que pertenezcan merecen protección

y por ello el gobierno vasco está finalizando el programa marco por el empleo y la reactivación económica dos mil diecisiete dos mil veinte como también se ha dicho del que será parte importante el plan estratégico de empleo a su vez será base para el desarrollo de los planes anuales de empleo gure ustez enplegua bere osotasunean aztertzea derrigorrezkoa da horregatik

jaunak aipatu egin du vemos más lógico y eficaz el entender y atender la situación globalidad como un todo haciendo hincapié en las circunstancias específicas que cada persona que cada colectivo vulnerable pueda necesitar de forma más concreta pero siempre entendiéndolo como parte de un todo y por eso creemos que es más

global el gobierno vasco está trabajando desde el primer día en mejorar las condiciones que permitan la reactivación económica y la creación de empleo así como que la tasa de paro descienda del diez por ciento para el año dos mil veinte y avanzamos por el buen camino si bien más despacio lo hemos dicho

de lo que nos gustaría a todos y a todas pero los datos publicados la semana pasada referidos al mes de octubre así lo avalaban también la cifra de ciento treinta mil cincuenta y seis personas paradas es la más baja

y los contratos indefinidos siguen al alza lo que evidencia en la contratación de mejor calidad que no es autocomplacencia pero que los datos también hay que tenerlos en cuenta no solo los malos también cuando alumbran cierta luz respecto a los parados de larga duración y la señora kortajarena lo ha mencionado en su discurso

a corroborar también una tendencia positiva dentro de la situación que usted

durante el último mes de octubre ha bajado más el paro de larga duración

en desempleo personas que estaban en el colectivo de larga duración que el de corta duración

respecto a la referencia anual se aprecia también una disminución mayor en el colectivo de larga duración con decremento del nueve coma diecisiete por ciento frente a la disminución del seis coma treinta y siete registrada entre los de corta duración seis coma treinta y siete frente a nueve coma diecisiete por ciento

por este colectivo de personas paradas de larga duración y que las medidas aplicadas van

es imprescindible optimizar e incrementar sus competencias gestionar y facilitar los recursos formativos más ajustados a la realidad y circunstancias personales de cada persona para todo ello es necesaria compartimos con ustedes la atención personalizada además también hay una apuesta fuerte por las empresas de

ya que pueden constituirse en un puente valioso entre la fase de recualificación y el acceso a un empleo ordinario

pues efectivamente señora kortajarena hoy

importantísimo es verdad yo creo que también todos los grupos lo dijimos aquí que es importante las prestaciones para con una persona

pero evidentemente el primer problema que preocupa a los ciudadanos a los vascos y al resto de los españoles es el empleo así se ponía de manifiesto en esas intervenciones que

de personas que se han quedado sin empleo y porque el empleo

además de conseguir los recursos necesarios para tener una vida digna va mucho más allá de eso y creo que ese objetivo es el objetivo que tienen las personas el encontrar un empleo y es el objetivo que deben perseguir

porque si evidentemente el desempleo es una cuestión preocupante en cualquier colectivo en el caso de los parados de larga duración se agudiza porque es un círculo vicioso cuanto más tiempo tardan en encontrar empleo

y la crisis ha agravado la situación de este colectivo ha generado

y por tanto de exclusión social

con los testimonios que ha dado y es verdad además de quedarse sin empleo yo creo que

de cuarenta de cincuenta años que llevan toda su vida trabajando y que además a esa situación

a sus años sin empleo y de impotencia por no poder volver a incorporarse al mercado laboral

están las grandes dosis de desesperanza que yo creo que es contra lo que debemos

ciento treinta mil cincuenta y seis personas estaban sin empleo en octubre en este dos mil diecisiete

de dos mil dieciséis ha descendido es cierto pero menos que la media nacional y por territorios el menor descenso se ha producido en álava

les ha venido bien el dato del último mes que ha descendido el número de parados de larga duración

hace diez años los parados de larga duración suponían el treinta y dos por ciento del número de parados hoy suponen el sesenta y dos por ciento seis de cada diez parados en euskadi son parados de larga

personas en euskadi son parados de larga duración y llevan más de dos años fuera del mercado laboral y como decía es un hecho que cuanto más tiempo se esté en el desempleo

públicos y llevar a cabo políticas públicas para encontrar una salida a esas casi

y yo creo que casi todos hemos dado los mismo

euskadi está a la cabeza de los parados de larga duración es cierto que ha descendido un punto los parados que llevan más de un año buscando empleo pero es que en el conjunto de españa ha descendido cinco puntos no lo décimos nosotros lo pone de manifiesto un informe que todos ustedes

en el informe labora de euskadi y según revela dicho informe que es relativo al tercer trimestre de este año y en base a los datos de la encuesta de población activa

al sesenta y tres coma setenta del periodo anterior sin embargo en el conjunto de españa ha caído desde el sesenta y uno coma veintitrés al cincuenta y seis coma dos

seis puntos y las razones también las daba la catedrática euskadi cuenta con una población envejecida

empleos que no requieran una alta cualificación porque

en euskadi y el tener un tejido productivo más avanzado juega en contra de esos desempleados según el informe este informe

en el desempleo por ello recomendaba en ese informe poner en marcha medidas integrales incluyendo una formación específica luego esto

si en euskadi los empleos requieren mayor cualificación será necesario poner los esfuerzos en cualificar a esos desempleados y además darles una cualificación

de nuestra comunidad y también como se decía aquí intentar de alguna manera certificar la experiencia que en muchos casos tiene para que

con la cualificación necesaria para volver al mercado laboral

que le dio a la interpelación de la señora kortajarena que decía la señora

que le parecía tarde yo creo que me parece oportuna conocíamos

como decía antes la señora artolazabal contestaba que

una de esas prioridades es evitar la cronificación y que las claves que se deben seguir estarán recogidas en la estrategia vasca de empleo

en planes y estrategias anteriores pero claro parece que lo que está en el papel no basta y que

la adopción a lo mejor de medidas distintas porque la situación sigue estando ahí seguimos estando como digo a la cabeza del desempleo de larga duración y este tema es verdad que lo hemos tratado en otras ocasiones en esta cámara

tuvo lugar una interpelación al entonces consejero señor toña que después dio lugar a una moción que es precisamente a la que se hacía referencia en la iniciativa

entonces en ese momento señalaba el consejero que la comisión europea había emitido una recomendación a los estados miembros para que implementasen medidas para lograr incorporar

y ya en ese momento ponía de manifiesto la necesidad de diseñar planes personalizados adecuados a esas personas con un itinerario también personalizado porque como señalaba antes en todos los planes en todas las estrategias como decía

de parados de larga duración tienen una atención específica es verdad y lo tengo que reconocer aquí que se arbitran medidas específicas para intentar rebajar las cifras

esas al menos en el papel están puestas pero lo cierto es que o bien no se llevan a la práctica o si se llevan desde luego no son suficiente porque como digo

tengamos los últimos datos de octubre pero lo cierto es que la media no desciende al ritmo del conjunto

al que lo ha hecho desde el inicio de la crisis el paro en general también se nos explicaba por parte de la consejera la importancia del acuerdo

aquí una referencia y es que son importantes pero este grupo en muchas ocasiones ha tenido que preguntar por ellos en esta cámara porque siempre tenían un retraso siempre tenían retraso en su resolución con lo cual al final el siguiente también salía con retraso

lo que se contiene muchas veces en los documentos y en los planes cuando pasamos a los hechos pues no parecen tener tanto efecto es cierto que

y entre ellos estaba el plan estratégico de empleo dos mil diecisiete dos mil veinte esta semana el martes la señora consejera ha anunciado que en un mes se aprobará ese plan estratégico de empleo dos mil diecisiete dos mil veinte

poco efecto va a tener en este año en ese plan como en los anteriores eso nos anuncia que va a tener un tratamiento específico colectivo como mujeres jóvenes y parados de larga duración

las medidas que estaban en los planes anteriores ver por qué no han cumplido sus objetivos

y lanbide en este momento no es un instrumento adecuado para la empleabilidad creo que de ningún parado pero

y no lo digo yo la señora consejera dijo el otro día que se van a aportar más fondos en este ejercicio precisamente para aumentar la empleabilidad de lanbide

de dicho instituto es necesario reconocer los errores yo creo que la autocomplacencia en estos asuntos no es buena y yo le veo a los grupos que apoyan al gobierno

mucha autocomplacencia hay que reconocer que algo no ha debido funcionar las tasas que tenemos son las que tenemos por lo tanto yo creo que habría que preguntarse si realmente se hace autocrítica se hace autoexamen y si se ve

si se van a tomar las medidas para que funcione porque por ejemplo se hablaba aquí de acuerdos interinstitucionales

que las lanzaderas de empleo en álava concretamente la de vitoria llodio y oyón han quedado doce plazas libres parece que esas lanzaderas

atractivas y adecuadas para encontrar empleo pues habrá que estudiarlo

a la señora consejera a veces más importante que la competencia es tener gestores competentes y creo que debieran preguntarse si realmente en este tema

y realmente se está siendo efectivo en la búsqueda de empleo para parados de larga duración pues yo creo que no y a la vista de los datos queda patente

que era posible hacer ese plan de choque y que era adecuado en cualquier caso la transacción más o menos contiene lo mismo
y nosotros vamos a apoyarla nada más gracias eskerrik asko llanos andrea

cómo no le voy a reconocer que usted conozca la situación de cerca usted vive en rentería y yo en loiola ya me entiende lo que quiero decir con eso todos y todas las aquí presentes conocemos muy de cerca esta situación no tenemos

voy a ser breve porque creo en mi anterior intervención al menos

de los argumentos de por qué nosotros considerábamos oportuna la iniciativa y explicar qué elementos nosotros queríamos introducir

de esta manera creo que tiene que ser consciente de que las dinámicas que su grupo y el grupo nacionalistas vascos

y actuando luego en bloque pues a veces nos complican también

aclarar un poco más la posición de mi grupo que creo que la he explicado al principio de mi anterior intervención nuestro grupo

añadidos de mejora y desde el primer momento trasladamos al grupo proponente nuestra disposición a que se negociase

en ese acuerdo porque la iniciativa o la enmienda

partido socialista y partido nacionalista vasco aunque luego nos pidan negociar por separado esa enmienda nosotros no teníamos tampoco ninguna objeción a su contenido

y a ser posible algunas de las cuestiones que yo he explicado con anterioridad y por eso yo he explicado que creo que ustedes han tenido vértigo podré estar en lo cierto o podré estar equivocado pero creo que ustedes han tenido vértigo a la hora de intentar llegar

y lo cierto es que en las explicaciones que han dado ambos grupos partido nacionalista vasco y partido socialista pues parece que estuviéramos casi absolutamente de acuerdo en lo que hay que hacer respecto a las políticas con los desempleados bien yo

que yo he mencionado he explicado por qué creo que hoy en día no se hacen así y creo que no se ha dicho nada al respecto no obstante

volvemos a tener este debate haremos todos y desde luego mi grupo se compromete a ello mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo eskerrik asko

hombre yo entiendo que a ustedes les pueda resultar lioso y que probablemente yo también tenga dificultades para explicarme como debiera o para hacerme entender pero creo que no es tan difícil

luego creo que lo primero que hay que hacer es saber distinguir entre el gobierno y los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno y nuestra dinámica de trabajo interna entre estos señores y la nuestra será la que sea pero yo cuando estoy negociando algo o cuando intento llegar a un acuerdo me pongo en contacto con todos me pongo en contacto con todos

pero que dentro de las discrepancias también sabemos llegar a acuerdos por eso estamos en un gobierno y probablemente si ustedes sí hubieran tenido voluntad de llegar a acuerdos con nosotros

con nuestro socio y hubiéramos intentado llegar a un acuerdo pero no ha existido esa posibilidad y usted señor hernández me dice es que tenemos dificultades pues

el problema ya no es mío es suyo se lo puedo asegurar es suyo y creo que no es el caso creo que somos

llegar a un acuerdo aunque tengamos diferencias entre unos y

si tengo vértigo o no tengo vértigo porque como no ha hablado conmigo no lo sabe

el ponerlo encima de la mesa como será oportuno también que este gobierno asuma su responsabilidad como lo está haciendo

en marcha herramientas como lo está haciendo porque ya se lo he dicho y se lo reitero de la misma manera que me puede parecer acertado que ustedes aquí intenten visualizar un problema que nosotros reconocemos que existe que nosotros también visualicemos y les digamos que todas esas medidas que ustedes están poniendo encima de la mesa ya se están haciendo

que podremos ganar en efectividad sin duda qué hay margen de mejora se lo he dicho en mi anterior intervención por tanto vamos a intentar que esas medidas sean lo más eficaces posibles y que entre todos con aportaciones de unos y de otros consigamos que verdaderamente las herramientas que ya tenemos en marcha sean las mejores posibles tenemos un reto

todos cada cual en la medida proporcional y en el papel

y en el gobierno yo señora kortajarena no he querido reivindicar ninguna bandera yo se lo puedo asegurar yo le he dicho que yo lo he vivido en casa que soy muy consciente y que por tanto por eso le digo que me parece muy oportuno lo que ha traído lo vivimos usted en su comarca yo en la mía otros en

social que está ahí y que creo que además

ha decidido que hay que modernizar lanbide que tuvimos ya un debate previo en esta cámara parlamentaria yo creo que todos expusimos muy a las claras qué concepto tenemos o qué objetivos tenemos dentro de lo que tiene que ser esa reforma de lanbide por tanto vamos a esperar que esa reforma se debata se ponga encima de la mesa la analicemos en profundidad y que a raíz de ahí implementado eso con el programa marco de empleo que también se podrá encima de mesa procuremos pues que la conjunción de ambas cosas sean una herramienta perfectamente

que nuestras herramientas o las herramientas que ponga este gobierno sean lo más eficaces posible gracias eskerrik asko andueza jauna arregi andrea zurea da hitza

respecto al tema del acompañamiento real y personalizado al que usted hacía mención sobre todo en el primer turno señor hernández estamos totalmente de acuerdo y lo decía yo también

a las circunstancias de esa persona y a sus circunstancias en concreto porque es verdad que no todos los parados

tenga que variar y yo creo que aunque como siempre sale también el tema de lanbide etcétera

que hay que mejorar que tenemos ahí también y vamos a hablar largo y tendido al respecto pero lanbide ya está

de forma personalizada tiene claro que hay que dar una atención lo más concreta posible a cada persona y sus circunstancias como digo

nos parece muy importante y adecuado y está trabajando tanto el departamento de empleo y política sociales en coordinación con el departamento

en este sentido y para que se homologuen porque evidentemente las personas que llevan muchísimos años trabajando qué van a tener que demostrar que saben hacer ese trabajo otra cosa es que haya que dar esa formación que sí que creemos que es importante otra formación más adecuada a las necesidades en un momento concreto también de lo que se está haciendo en las empresas para poder facilitar

todos y todas queremos se están dando pasos que están mejorando que esperemos que así y todo sigamos avanzando

la situación de este colectivo hombre señora llanos me ha parecido cuando menos

les han venido bien esos datos nosotros no hemos presentado la iniciativa la iniciativa

el partido eh bildu y ni nos han venido bien ni nos han venido mal yo creo que los datos

muestran esa tendencia son positivos dentro de la situación a la que usted hacía referencia pero creo que a quien vienen bien o menos mal es al colectivo de personas por lo tanto cuando menos me ha parecido desadecuada vamos a decir y luego se

diferentes datos que sí es cierto lo que usted ha dicho pero también

informe de la señora de la rica también se dice que el balance en euskadi se advierte una mejor situación laboral con una mayor proporción de ocupados y menor proporción de parados

la tasa de desempleo es de once coma veintitrés que se encuentra entre las tres más bajas del estado bueno los datos como siempre aquí podemos resaltar unos

son la situación está mejor de lo que estaba vamos avanzando

siempre se dijo desde el primer momento no en esta legislatura sino en la anterior que ojala fuera lineal y fuera siempre hacia arriba pero hay veces bueno pues que hay esos dientes de sierra que entre todos y entre todas y con las políticas que viene

este gobierno pues esperemos darle la vuelta y que sean siempre en línea ascendente y la situación mejore para todos y para todas porque eso va en
beneficio de la sociedad de euskadi eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea

gracias de nuevo señora presidente y aunque no creo que agote todo el tiempo me resulta más cómodo hablar desde aquí porque

no me corresponde a mí tenga por supuesto que si yo llevo una iniciativa y quiero llegar a un acuerdo hablaré

permítame la expresión que se la ha agarrado un poquito con papel de fumar porque yo comprendo que es difícil de explicar porque una iniciativa

sino prácticamente igual era la enmienda que el partido socialista de euskadi y eh bildu firmaron hace dos años y que

entonces ustedes estaban en la oposición ahora están en el gobierno y lo que antes era que no hacía nada

que sí lo es yo de todas formas tomo nota y por lo que a mí respecta y si yo tengo una iniciativa tenga por seguro que llamaré no solo a usted sino

a cualquier miembro del grupo socialista y

señora arregi por supuesto a quien mejor le ha venido bien es a esas mil doscientos personas

conseguido dejar de estar en el desempleo pero reconózcame usted es de bilbao

que ha sido declarada mejor ciudad europea dos mil dieciocho para felicitar a bilbao pero vamos de bilbao bilbao porque usted sale aquí

y no es así no es así me dice no es que los datos

ya pero es que nosotros ya partíamos euskadi partía al inicio de la crisis con datos de desempleo inferiores a la media de españa pero es que el comportamiento

cuando se ha destruido empleo se ha destruido más que en el resto de españa

menos y a un ritmo más lento que el resto de españa y en concreto en los parados de larga duración se lo he dicho seis puntos de diferencia

hemos pasado de antes de la crisis tres de cada diez desempleados

seis de cada diez luego es verdad somos de bilbao somos muy buenos pero hay algunas cosas que no debemos estar haciéndolas bien y de lo que se trata para mejorar hay que reconocer lo que no se está haciendo bien y ustedes son los maestros de cuando hay que reconocer lo que no está haciendo bien el gobierno de españa los primeros de la fila ahora cuando hay que reconocer lo que

ya es más complicado y se lo digo para mejorar primero saber lo que no se está haciendo bien y desde luego con los parados de larga duración algo

por qué una iniciativa como es esta la del plan de choque no se puede

adecuada porque evidentemente la situación es la que es el paro de larga duración está enquistado en este momento en euskadi y ya

tiempo para hacer las cosas se lo decía la semana pasada desde el año dos mil diez tenemos las competencias de las políticas activas de empleo desde el año pues bueno el paro de larga duración vemos cómo está

desde el año dos mil diez llevan para hacer una política global del empleo de las personas con discapacidad

de decreto de centros especiales de empleo yo entiendo que ustedes tiempo necesitan pero es que

son los parados de larga duración por eso yo creo que es absolutamente adecuado

desde mi grupo habíamos registrado esta proposición de ley porque creíamos que es el momento

ahora se daban las condiciones para que este parlamento como institución democrática que es cumpliese con una

obligación moral e histórica con respecto a las víctimas de las injusticias de la dictadura franquista

pensábamos que la ley que podía ver

cumplía como decía un papel histórico y que era obligación de este parlamento impulsarla por varias cuestiones pero entre ellas porque si nosotras y nosotros estamos hoy aquí y podemos defender nuestras ideas ante los otros grupos en esta cámara

que sufrieron aquella injusticia que intentamos reparar jurídicamente como ustedes saben

desencadenó una cruenta guerra civil que duró hasta el año mil novecientos treinta y nueve con posterioridad y tras el triunfo del bando franquista sobre la legalidad vigente representada por la constitución de mil novecientos treinta y uno

se impuso una dictadura durante casi cuatro décadas que devino en masivas sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos estas violaciones de derechos humanos también de derechos civiles y políticos formaron parte de una política planificada y consciente de represión para acabar con toda forma de oposición resistencia disidencia

con el régimen impuesto así cientos de miles de personas en el estado y en euskadi fueron perseguidas por su filiación política o sindical por sus ideas

en gran medida estas violaciones de derechos humanos se realizaron a través de las propias instituciones del estado no solo pero también de las instituciones del estado en particular de tribunales y consejos de guerra de hecho la represión se llevó a cabo tanto durante la guerra

buena parte de esta represión se realizó siguiendo bandos de guerra decretos y leyes que emanaban directamente del nuevo poder constituido poder ilegítimo poder ilegal en los que los delitos tipificados los procedimientos seguidos y las garantías procesales

el derecho natural las convicciones de ginebra o con posterioridad la declaración universal de derechos humanos de mil novecientos cuarenta y ocho en euskadi la aplicación de esta nueva legalidad ilegítima recayó en la auditoría de guerra del ejército de ocupación llamada posteriormente auditoría de guerra de las sexto región militar a pesar de que a nivel estatal

de veintiséis de diciembre de la memoria histórica la conocida ley de memoria histórica estos procedimientos sanciones y condenas del franquismo no se declararon nulas a pesar de ser una de las reivindicaciones históricas de las víctimas y de los colectivos y asociaciones memorialistas

poderes públicos tanto el comité de derechos humanos de las naciones unidas como del relator especial sobre la promoción de la verdad la justicia la reparación y las garantías de no repetición

en el que señalaba que hay que identificar mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales de derecho

se constata por lo tanto en nuestra opinión la necesidad de avanzar decididamente en este ámbito en el actual contexto democrático el restablecimiento de la dignidad de las víctimas es un camino para la verdad para la justicia para la reparación y para las garantías de no repetición por este motivo

instruidos en el país vasco desde el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis hasta diciembre de mil novecientos setenta y ocho por la auditoría de guerra del ejército de ocupación

la nulidad de origen de los procedimientos y de las resoluciones sentencias condenas y sanciones que emanan

no debe comportar ningún problema para que la ley constate y declare la nulidad de aquellos hechos y busque también

esta ley establecer un mecanismo administrativo ágil para obtener certificación individualizada de esta circunstancia que la ley constataría y declararía dado que los procesos y resoluciones dictadas por los tribunales militares fueron públicos para hacer efectivo el valor reparatorio habilitaría a gogora instituto de la memoria la convivencia y los derechos humanos para que elabore y publique una lista de procesos y sentencias creemos que ha llegado el momento de asumir la responsabilidad histórica ante las víctimas de aquellos procesos reparando los abusos cometidos por el régimen franquista contra la legalidad judicial y procedimental y haciendo las reparaciones exigidas por las personas represaliadas la sociedad vasca y las instancias

nosotros registramos esta proposición de ley absolutamente convencidos como decía al principio

adelante y para que esta cámara hoy tomara en consideración la iniciativa

para permitir que la ley pudiera ser mejorada si es que puede ser mejorada

enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios y lo hacíamos convencidos de esto porque pensamos que en la pluralidad ideológica que hay en esta cámara hay mayoría suficientes e incluso diría que podría haber habido unanimidad

esta proposición de ley basándonos en los últimos hechos que han pasado recientemente y que ustedes conocen pensamos que quizás no hay una discrepancia de fondo y por eso lamentamos profundamente que hoy esta proposición de ley no vaya a cumplir el primer trámite

creemos y así lo décimos que es un tremendo error la opinión emitida por el gobierno vasco en cuanto

autónoma pensamos sinceramente que no han tratado la cuestión con suficiente

sin ningún entusiasmo creemos que hay razones de sobra para pensar que esta ley no excede las competencias de la comunidad autónoma

y además lo constatamos en los hechos como ustedes saben en el parlamento catalán se aprobó hace ya unos meses muy similar a esta tan similar que mi grupo cuando registró esta proposición básicamente lo que hizo fue trasladar aquella ley adaptándola

y esto no es casual esto es porque aquella ley no era cualquier ley ni había surgido de cualquier forma aquella ley fue aprobada en el parlamento catalán

un proceso donde todos los grupos estuvieron pendientes y preocupados de evitar que esa ley pudiera ser

y eso motivó que finalmente aquella ley fuese aprobada una ley de reparación jurídica de las víctimas de la dictadura franquista

una ley que fue aprobada por todos los grupos que ningún partido

ha impugnado en el tribunal constitucional una ley que ningún fiscal ha impugnado ante el tribunal constitucional para nosotros eso son garantías

como mínimo para ser valientes iniciar el trámite porque además lo traemos

puede ser diferente a la proposición inicial que nosotros traemos

el miedo las reservas y la negación que hoy puede haber a que iniciemos los trámites para esta ley la ley catalana hoy en día está en vigor está en vigor y nadie la recurre y esa es la mejor prueba de que se puede hacer y hoy creo que este parlamento desgraciadamente por lo que me trasladan los grupos parlamentarios algunos de ellos

que es como decía un deber histórico y moral para nosotras y nosotros la ley que ya está aprobada en cataluña y que nosotros queríamos que viera la luz

ya ha empezado a dar resultados para la gente para las víctimas ya se han

su reparación jurídica permítame brevemente la primera persona que recibió esta certificación fue el periodista

un referente periodístico local y vecinal de barcelona sometido a un consejo de guerra sumarísimo julio de mil novecientos setenta y cinco por haber publicado un artículo titulado

decía que era evidente que los tribunales habían actuado contra la legalidad y habían vulnerado el derecho

yo lamento muchísimo que no haya habido voluntad y no solo eso que haya habido en mi opinión otras cuestiones incluso cobardía a la hora de ser valientes e iniciar el trámite que como digo podía haber sido modificado en la proposición de ley en el procedimiento

porque hay miles de vascas y vascos y personas del conjunto del estado que están esperando hace mucho tiempo

más adelante si la ley saliera adelante pero hoy no podemos tener ese listado de víctimas pero a mí me gustaría hoy poner cara a una persona muy especial que no tiene especial relevancia o mayor relevancia con respecto a otras víctimas de la dictadura

miguel usabiaga esta persona es su padre que es

le conozcan él ya no va a poder ver en vida

ley si hubiera salido adelante porque falleció desgraciadamente hace dos años pero yo estoy seguro que su viuda bittori y que su hijo miguel y con ellos

en el conjunto del estado y también en euskadi estarían de acuerdo en que hoy deberíamos haber sido valientes y habernos atrevido a superar posibles dudas porque como digo hay argumentos

para estar convencidos de que nadie iba a recurrir esta ley tal y como ha pasado en cataluña marcelo fue condenado en abril de mil novecientos treinta y nueve además por unos hechos que no cometió como certificó

mientras se desarrollaron los hechos de los que se le acusaba aun con ello fue condenado a treinta años de prisión tuvo una vida dura

se escapó de prisiones fue nuevamente condenado y en total pasó más de veintiuno años en las prisiones de franco este ciudadano hernaniarra perdón

es uno más son miles los que esperan una ley como esta y creo que no van a entender que no seamos valientes

a enfrentarnos a dudas jurídicas que no se sostienen

fue simplemente condenado a una vida de prisión por tener un carnet como este es mi carnet del partido comunista la única razón por la que una persona tuvo que pasar veintiuno años de su vida en prisión pero podía haber sido este carnet podía haber sido un carnet de la cnt de la ugt de anv del partido nacionalista vasco desde luego y del partido socialista

la verdad es que lamento muchísimo porque creo que no hay argumentos suficientes para que no iniciemos los trámites de esta proposición de ley de verdad que lo lamento muchísimos y creíamos por un momento además que iba a poder creo que hubiéramos sido valientes aunque haya un criterio desfavorable del gobierno

los gobiernos también se equivocan y creo que hoy tocaba ser valientes y haber hecho lo que ya han hecho en otros sitios y lo que no puede ser impugnado

y que tiene que haber acuerdo entre todos los partidos políticos si queremos de verdad poner en valor lo que llamamos democracia tenemos que resolver

quiero mostrar mi perplejidad por el criterio desfavorable del gobierno vasco a esta proposición de ley un criterio que no logro entender a la vista de cuatro argumentos o cuatro circunstancias que quiero exponer la primera

como no podía ser además de otra manera con iniciativas conmemorativas del ochenta aniversario

y por fin hoy una iniciativa sustancial con cierto contenido material con cierta enjundia que se trae a este parlamento

galanta daukagu tercero porque la actitud que adopta el gobierno vasco

es la que dicen que no se puede hacer algo mientras otro al lado

ya lo está haciendo dirán que es una obsesión tal vez también el señor

lo están haciendo han tomado esta decisión y la están poniendo en marcha y es que tiene la misma competencia o la misma falta de competencias que tenemos nosotros y nosotras y además como se ha comentado anteriormente lo han hecho por unanimidad y además el tribunal constitucional siempre bien apostado para tirar contra cualquier decisión que no quepa en esos estrechos márgenes de la constitución no dicho nada no ha puesto ninguna objeción y hoy me pregunto resulta que va a ser más estricto a la hora de censurar competencias propias el gobierno vasco que el tribunal constitucional porque hoy llego a la conclusión de que sí está siendo más estricto pero no es solo que cataluña haya adoptado una decisión calcada para traer la nulidad de condenas de tribunales franquistas

adoptar decisiones sino además está ejerciendo esa decisión y yo también les quiero mostrar algo generalitat de cataluña

entre les cuells i consta el procediment contra lluís

jover yo considero este texto un documento histórico esta resolución este reconocimiento

de dignidad presuntamente no se puede hacer aquí y sin embargo la generalitat ya está emitiendo este tipo de

no lo quieren hacer ustedes señores del gobierno vasco porque yo quisiera que ustedes quisieran que libraran una declaración en los mismos términos a nombre de cándido saseta

de los dieciséis de azazeta de los catorce de santoña de txiki o cómo no de marcelo usabiaga hemen gure artean dagoela agur eta ohore quisiera que se les otorgara el reconocimiento

golpe de estado y por todo ello nula de pleno derecho

certificados como este y aquí todavía no tenemos el lista de a quién deberíamos de

con la falta de voluntad que se va a expresar ante esta ley estamos todavía más lejos de hacerlo lo cual considero que es una verdadera

buenos días gracias presidenta consejeros

bien es loable la voluntad del proponente pero no es un problema de valentía desde nuestro punto de vista es un problema de competencias y es un problema de ubicación de legalidad claro que se pueden declarar nulas las sentencias de tribunales y órganos

no la puede declarar desde nuestro análisis jurídico y desde nuestro punto de vista una ley del parlamento vasco en ningún caso y por ello sería un fracaso aprobar

primero porque se aprobaría una ley para una cuestión en la que este parlamento no tiene competencia y sería imposible de aplicar y segunda porque provocaría una frustración en personas que de verdad puedan buscar la nulidad de las sentencias judiciales del pasado

a su pretensión desde luego nosotros no entramos en el fondo del asunto pero sí en el instrumento empleado para la pretensión del proponente además esto no es una proposición no de ley es una proposición de ley

un cauce un recorrido que nosotros no vemos en esta iniciativa un recorrido que esta iniciativa entendemos nosotros desde el análisis reglamentario jurídico competencial legal que hacemos de esta iniciativa un recorrido que no puede transitar por esta cámara claro que se han producido

claro que reconocer ilegitimidad y falta de garantía en muchos juicios del pasado pero hay que arreglar las injusticias que se hayan podido causar por el procedimiento adecuado que será a través de la actuación judicial y de los procesos de revisión y las correspondientes sentencias declarativas de la nulidad de las sentencias anteriores eso también previa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que establece los motivos para poder anular una sentencia e introducir nuevas causas de revisión o si no una ley general que declare nulas las actuaciones judiciales o una reforma de memoria histórica que se ha citado pero no una ley de este parlamento tendría que ser una ley de las cortes generales una ley del congreso de los diputados pero también de los discursos que se han planteado parecería que no se ha recorrido nada pero lo fundamental

está bien claro que tienen la ley cincuenta y dos barra dos mil siete que declara la ilegitimidad de procesos

órganos penales o administrativos que durante la guerra civil se hubiesen constituido para imponer por motivos políticos ideológicos o de creencias religiosa condenas o sanciones de carácter personal así como

que por ser contrarios a derecho y vulnerar las más elementares exigencia

en todo caso la ilegitimidad del tribunal de represión de la masonería y del comunismo el tribunal del orden público así como los tribunales de responsabilidades políticas y consejos de guerra constituidos por motivos políticos ideológicos o de creencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo dos de la ley de memoria histórica y también dice

que se declaran ilegítimas por vicios de forma y de fondo las condenas y las sanciones dictadas por

sea lo que usted pretende ya se ha declarado ya se ha declarado eso sí el problema es que

la palabra que emplea la ley para desarbolar todas esas sentencias y todo ese trabajo de los tribunales es un término de raíz política más que jurídica y ello aún puede causar problemas de aplicación ante la justicia eso hay que reconocerlo yo le he hablado de que es necesario quizás algunas otras reformas que abordar pero este no es el sitio señor hernández este no es el sitio y por eso hemos votado en contra

otros procedimientos otras mayorías y otras posibilidades del cambio de legalidad ahí está lo que dice la ley lo que recuerda la ley y

para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la guerra civil y el franquismo hay que buscar los cauces oportunos y una ley autonómica

no es el cauce oportuno no es el propósito para hacer efectiva esa nulidad no puede serlo no lo es la pregunta sería

no sería perfectamente inútil porque sería perfectamente inaplicable por eso nos hemos opuesto a la toma en consideración de esta iniciativa las posibilidades están en otro lado y eso sí algunos condenan el juicio la sentencia

sin embargo ni una palabra con fernando buesa

o con enrique casas ex compañeros de esta cámara muchas gracias lo digo por aquel eskerrik asko barrio jauna sánchez andrea

gracias presidenta el grupo socialista ha votado en consonancia con su voluntad de

los servicios jurídicos del gobierno vasco han emitido criterio disconforme por razones estrictamente técnicas pero que políticamente creemos que podemos resolver

el camino de reconocimiento de esas víctimas lo empezamos precisamente desde el gobierno socialista

idoia mendia en el desarrollo de una ley aprobada poco antes en el congreso no sin poco esfuerzo y de la mano de otro socialista vasco el entonces

entendemos las cautelas de los servicios jurídicos del gobierno vasco actual sin perjuicio del demostrado compromiso de la protección y defensa de las víctimas

para no generar frustración por la posible interpretación competencial que se pudiera hacer vista la falta de voluntad del gobierno de rajoy

como acabamos de comprobar con la ley de reconocimiento de las víctimas policiales y a pesar de esos reparos que conocíamos fuimos capaces de mejorar y acordar esa ley

los socialistas tenemos una concepción ambiciosa y útil del autogobierno solo exprimiendo nuestras competencias hemos conseguido cosas tan importantes para la ciudadanía como la compensación del repago farmacéutico el derecho a la vivienda convertir el derecho subjetivo

eso es lo que explica nuestra posición insisto en que teníamos sino hubiera sido por el rechazo que acabamos de ver una oportunidad de corregir

en la ponencia que debía abrirse en cualquier caso los socialistas sí vemos que hay precedentes que debían avalar la procedencia legal y competencial

porque coincide con la ley aprobada en cataluña con el voto incluido del pp

que de este parlamento haya llegado a salir algo que no se cuestiona la legalidad y con ese grado de apoyo ya nos parece a tener en cuenta porque lo que se hace es deducir no declarar con el proyecto que nos había traído

originaria sobrevenida de todas las sentencias y resoluciones de los casos instruidas y de los consejos de guerra dictado por causas políticas en cataluña

no se agota con el objetivo de esta ley diría más que incluso los objetivos de esta ley pueden ser ratificados y dotados de mayor y mejor eficacia cuando se aborde esa cuestión a través de una proposición de ley en el congreso de los diputados

razón añadida para que no hayamos querido obstaculizar esta proposición pero que pueda haber

que lo que se pretende en esta proposición no sea válido legal ni positivo ello a los efectos de atender a los derechos de justicia reparación verdad

de no reparación de las víctimas de la guerra civil y dictadura franquista quienes impulsamos e hicimos posible la ley de memoria histórica tenemos la obligación junto a su reivindicación de reconocer diez años después de su aprobación

de sus condenas y sanciones no ha sido suficiente para cerrar una herida humana y social de las víctimas

es también una obligación para los socialistas y para todos los vascos una obligación para todos aquellos que aspiramos a un futuro más próspero

yo sé que el gobierno vasco comparte empezando por el lehendakari quien lo ha subrayado en varias ocasiones con orgullo comparte que en esta materia no caben diferencias ideológicas y partidarias porque todas y todos nos sentimos

por un interés de país estamos convencidos que entre todos superaremos las dudas y cuestionamientos que nos han llevado a no encontrarnos en este debate no tengo ninguna duda porque estoy convencida de que los ciudadanos y ciudadanas

nos representamos queremos repetir en un próximo momento una expresión similar dignidad compromiso y generosidad

idéntica en el contenido a la que hoy no ha sido tomada en consideración esperemos que en un futuro próximo quienes lo padecieron

no deben de ser simplemente declarados ilegítimos como la ley de memoria de hace diez años

estamos también completamente de acuerdo en que las sentencias dictadas por esos tribunales no solo deben ser ilegítimas como la ley de memoria dos mil siete

de todo derecho evidentemente si los tribunales franquistas de la dictadura no los reconocemos y les tachamos de ilegales e ilegítimos todas sus sentencias evidentemente

pero aquí estamos ante un problema de forma estamos

incluso con el texto articulado pero hay un problema de forma que es que nos hace que votemos en contra de esta ley

un fondo y una forma la pega es que este asunto es un asunto muy visceral y hay que cuidar muy bien yo por eso quiero defender y dejar claro cuál es el voto

esa propuesta de ley no toca absolutamente para nada al fondo tenemos dos vías la vía catalana y la vía del criterio desfavorable del gobierno vasco cuyo párrafo voy a leer aunque me reconocerán usted

dice que el presente acuerdo pese a su innegable deseo reparador

órganos judiciales constituidos en el pasado y en cuanto a deducir que sean o no nulas las resoluciones que

por una parte tenemos el recuerdo el sentimiento la ideología

en el primer asunto estamos repito porque voy a repetirlo muchas veces el tiempo que me queda al cien por ciento de acuerdo aplicando nuestra ideología nuestro sentimiento

pero luego ante las dos vías que tenemos abiertas la vía catalana y la vía de la declaración

hemos elegido evidentemente la del gobierno vasco el tiempo dirá cuál de las dos tiene más recorrido

pero ahora evidentemente nosotros tenemos que afirmar y reafirmarnos en el criterio desfavorable del gobierno vasco y como ejemplo para amparar este voto nuestro negativo hoy pondré lo que también se ha dicho antes en la tribuna la actividad

ha hecho decenas de actos durante este año todos llamados y presididos por el lehendakari urkullu y organizados por gogora empezamos el año

haciendo un homenaje a los dieciséis fusilados entre ellos el alcalde democrático de gasteiz siguió santoña siguieron muchos más y yo nunca olvidaré

una pareja de octogenarios que tenían una bandera que era mitad ikurriña mitad republicana tenía también pegatinas rojas y negras de la cnt y la fai ahí había como en todos los actos que ha montado lehendakaritza este año

había banderas comunistas anarquistas socialistas ikurriñas republicanas

de la intención y de lo que el gobierno vasco ha hecho durante este año y durante

este es un tema que he dicho antes que es muy fácil de manipular mañana puede que haya un titular diciendo el pnv votó en contra de y por eso quiero repetir por cuarta vez en cinco minutos lo que he dicho

en el fondo el cien por ciento completamente de acuerdo no tenemos ningún problema en la exposición de motivos en los antecedentes e incluso en el texto pero formalmente estimamos que desde el punto de vista jurídico frío y legal

presentamos esta iniciativa sobre la accesibilidad en los centros hospitalarios en la comunidad autónoma del país vasco que comprende no solo los centros de

los centros de la red concertada y tengo que lamentar que a la enmienda de transacción que se ha firmado y que se ha llegado a un acuerdo pues no se haya podido finalmente sumar los partidos que

cuando teníamos una aproximación a un acuerdo prácticamente cerrado y en el último momento

de por qué cuando el consejero el otro día en la propia comisión de sanidad hace referencia a que este tema es un tema importante que se va a habilitar una consignación presupuestaria

a la problemática en relación a la accesibilidad a los centros hospitalarios en la comunidad autónoma del país vasco pues cuando hoy

un acuerdo que además yo creo que era muy positivo en el último momento pues el gobierno se ha desmarcado de dicho acuerdo esperemos

no tiene explicación que un acuerdo que se hacía eco de las

en relación a la elaboración de una estrategia por parte del gobierno vasco en relación a la accesibilidad a los centros hospitalarios en la comunidad autónoma vasca y también una iniciativa

planes de accesibilidad en aquellos centros hospitalarios que no tienen a día de hoy un plan específico

radica el problema cuando además finalmente en la enmienda de transacción

todas las sugerencias y las propuestas que nos ha hecho el grupo nacionalistas vascos no entendemos el último portazo de este gobierno a un acuerdo en materia de accesibilidad

muchas cuestiones también en relación a las negociaciones porque obviamente cuando una negociación parece que va a dar sus frutos en el último momento se le da carpetazo creo que además a un colectivo que ha trabajado en este informe pues de forma

muy con mucha muy codo a codo con el propio

zela cuando hablamos de personas que tienen problemas de acceso a los centros

vasca estamos hablando de problemas en el ámbito externo en todos los itinerarios de acceso a los propios hospitales tal y como recoge

el acceso también por las propias entradas de los hospitales cuando estamos hablando también de accesibilidad y problemas de accesibilidad que no solo nos referimos a los colectivos

sino también a personas que tienen problemas de visión o problemas de audición como ha quedado claramente recogido en este informe decía que también

a los problemas de accesibilidad en el ámbito externo al propio

el acceso a las salas lo que son las salas de espera las salas decía de diagnóstico de realización

claramente recogido en el informe del ararteko

tratado a propósito de muchas iniciativas en esta cámara en el ámbito de las comisiones en el ámbito del pleno por eso mi sorpresa que el gobierno

no haya posibilitado que lleguemos a un acuerdo en esta cuestión todos somos conscientes de las dificultades

dificultades en la movilidad comunicación y comprensión por eso el propio ararteko cuando hablaba de problemas en la accesibilidad hablaba de estas tipologías básicas

a dieciséis hospitales de la red pública doce hospitales concertados y ocho hospitales psiquiátricos y siete servicios de osatek

el diagnóstico que se realiza en este informe concluyéndose las carencias que existen en el ámbito de la accesibilidad en los distintos aspectos que he señalado

también la propia movilidad entre los edificios del mismo complejo hospitalario

con las propias asociaciones que están detrás de todos estos con personas con discapacidad y por lo tanto creo que en ese sentido se ha hecho un trabajo minucioso se habla de la carencia de planes y en ese sentido se señala que solo hay un hospital que tiene un plan específico de movilidad que es el hospital de zumárraga y nosotros lo que pretendíamos con la iniciativa que presentábamos la proposición no de ley era

elaborado ya y realizado por el informe extraordinario del ararteko que se constate también que las mejoras realizadas sí que es cierto que por ejemplo en el hospital

último que se ha inaugurado el hospital urduliz pues ahí ha habido mejoras sustanciales pero que en los hospitales

más antigua pues hay carencias significativas también nos parece importante que en la elaboración de esa estrategia que propone

el ararteko y que nosotros lo que planteamos en nuestra iniciativa aparte de ese diagnóstico se haga una planificación

acciones que se van a realizar y también con el desarrollo del cronograma

su ejecución y por otra parte nos parecía importante también que se haga ese plan de accesibilidad en aquellos centros que como digo son la mayoría o la inmensa mayoría dado que solo tiene un plan de accesibilidad específico el centro de zumárraga en línea con lo que estábamos trabajando

específicamente con el grupo al cual pertenece el consejero el partido nacionalista vasco pues habíamos hecho mucha aproximación prácticamente estaba cerrado el acuerdo en relación a que el gobierno vasco elabore una estrategia corporativa de accesibilidad integral incluso este término se ha introducido

del partido nacionalista vasco que la elaboración de esta estrategia se colaborara con las instituciones locales y colectivos de personas con discapacidad también que se incluyan

y que se elabore el diagnóstico previo que además entiendo que no puede haber mucho problema en elaborar por parte del gobierno un diagnóstico previo cuando

el ararteko pues ya ha realizado un diagnóstico se trata de tener en cuenta este diagnóstico añadir aquellas cuestiones que el departamento considera que son susceptibles de ser añadidas por otra parte pedíamos una relación de las actuaciones

de desarrollo de dichas actuaciones y obviamente las consignaciones presupuestarias para

pues qué menos que hablar de todo ese conjunto de acciones a realizar

en el seno de la propia estrategia que recojan el presupuesto que acompaña

de las distintas actuaciones sabemos muy bien el compromiso por lo menos en relación a las manifestaciones que todos los que estuvimos en la comisión del otro día de salud señaló el propio consejero por eso me sorprende y nos ha sorprendido a este grupo de forma clamorosa y cosa que lamentamos

que creemos que es absolutamente sensata que pide cosas que tenía que estar en disposición de hacer el gobierno y cuando el gobierno además se ha comprometido

en esta materia en materia de accesibilidad incluso hemos introducido un párrafo específico en relación a la elaboración de los planes de

y también que en esa estrategia se tengan en cuenta las medidas que resulten de los grupos de trabajo

de la salud comunitaria conformadas en las organizaciones sanitarias integradas en las osi

esta previsión dado que el propio consejero en la comisión hizo referencia a esta cuestión en su propia comparecencia y finalmente

por parte de las administraciones públicas de las previsiones o actuaciones

del año noventa y siete este es el acuerdo que hasta última hora parece que era posible con el partido nacionalista vasco y el partido acuerdo que estábamos negociando con la portavoz en esta materia del partido nacionalista vasco

pendientes de plasmar la firma y en el último momento el gobierno ha dicho que no a este acuerdo yo espero señora

que usted explique claramente dado que apoya al gobierno y al consejero en este caso que nos expliquen claramente cuáles son las razones finalmente

a su grupo a no apoyar este acuerdo que es el que estábamos trabajando y como digo que estaba pendiente de estamparse simplemente la firma de todos los grupos

la firma de aquellos grupos que yo entendía que teníamos el compromiso adquirido y por lo tanto

yo tengo que decir que lamento profundamente porque me parece que era un asunto en el que teníamos posibilidades de avanzar el pasado febrero también

y se aprobó por unanimidad por parte de todos los grupos por lo tanto entiendo que es una materia suficientemente sensible para luego cuando nos ponemos a redactar

y obviamente no hemos puesto todas nuestras reivindicaciones hemos hecho un esfuerzo por llegar a esta

este acuerdo lo que no puede ser y creo que es una contradicción absoluta que se venga a la comisión hace dos días de presupuestos se señale que es una cuestión que preocupa al gobierno en relación al informe

oportunidad de plasmar esos compromisos en cuestiones concretas y en un acuerdo concreto

nacionalista vasco se haya desvinculado de este acuerdo creo que

salvo que el partido nacionalista vasco los grupos que apoyan al gobierno me estoy refiriendo expresamente al grupo nacionalista vasco porque es el partido con el que se ha producido la negociación puesto que el consejero pertenece

un buen acuerdo yo creo que es un avance significativo y además en línea con un informe que creo que ha conllevado un esfuerzo importante

hace poco presentó este informe todos tuvimos ocasión también de plantear nuestras reflexiones de aclarar o plantear nuestras dudas y el ararteko

señores espero que por lo menos se abstengan para que salga este acuerdo

compañeros y compañeras parlamentarios consejero consejeros hace unos días estuve con mi amiga karmele

tetrapléjica hace años funcionaria de la administración pública y le dije

estas cuestiones de la accesibilidad de un excelente informe que nos ha presentado el ararteko

incidir en la conciencia en la sensibilización de mis compañeros y compañeras parlamentarias y me dijo bueno

que le conoces bien o a los equipos directivos de los hospitales o

o a los técnicos de calidad de los hospitales que entren en un hospital y

buenas para ir a las consultas de ginecología

y a ver qué pasa o que se tapen los ojos buenas para ir a

y luego que digan lo que han sentido o que se tapen los oídos e intenten descifrar si su médico de

o su médico especialista le informa de las orientaciones terapéuticas que siempre hay en toda consulta

eso es mucho mejor que cualquier reunión cualquier entrevista con colectivos de afectados

o cualquier proposición no de ley que salga del parlamento vasco así lo comento realmente no hay mucho que decir muy brevemente

cumplir las proposiciones no de ley insisto que este parlamento por amplio consenso aprueba

y que aquí fue aprobada sobre el tema el quince de febrero de mil novecientos noventa y siete y luego recordar algunas cuestiones

que discutimos ya en la comisión la semana pasada voy a resaltar cuestiones que ya he comentado y que me parecen especialmente relevantes

la primera cuestión en el tema de la accesibilidad a los centros sanitarios

mucho interés para todos y para todas abrir canales de comunicación permanentes entre los equipos directivos los técnicos y las técnicas de calidad

los y las profesionales sanitarios y las personas y colectivos afectados tiene que ser una verdadera autopista la relación

que tienen que ver con la elaboración de los planes de accesibilidad de cada centro es importante

mejorar la cultura democrática de las organizaciones sanitarias para conocer los problemas de colectivos como este la segunda cuestión que nos llamó la atención del informe del ararteko es que claro aquí estamos hablando de comunicación exterior comunicación interior comunicación dentro de los hospitales

y unidades concertadas en mi opinión hay un problema de tipo institucional de coordinación institucional

o nuevo tenga pocos problemas de accesibilidad interior y tengan más

más ancianas de nuestra red de servicios hospitalarios y sanitarios en su conjunto no es menos cierto que si no hay una coordinación adecuada

accesibilidad transporte frecuencia puntos de comunicación el asunto no funciona como bien se ha señalado en los resultado ya del informe del ararteko

hay que combinar adecuadamente la coordinación interinstitucional para mejorar los procesos de comunicación y accesibilidad interior y exteriores de nuestros centros sanitarios

es normal que auxiliares celadores médicos

que no ven a personas que no oyen o a personas con movilidades físicas reducidas cuando hay barreras a los servicios a los centros

destacar igualmente la dificultad real de algunas pruebas diagnósticas por ejemplo el último contacto que tuve yo

con nuestros ambulatorios de osakidetza es que me fui a hacer una audiometría

los debates de este parlamento que no tenemos que perdernos los detalles

y le dije a la enfermera muy atenta y amiga mía

no aquí no podemos hacerle una audiometría se la hacéis fuera

hay contaminación acústica no tenemos equipo y en el hospital

no estoy segura también me hice un par de pruebas

y una resonancia en osatek en aquellas cabinas no cabían sillas de ruedas donde yo estuve en mi ambulatorio en el que me toca

objetivos de accesibilidad sino también las consultas ginecológicas karmele me comentó específicamente para las revisiones ginecológicas de personas tetrapléjicas o de personas con movilidad reducida

es un asunto muy complejo es una conquista del espacio lugares de sala de espera y sobre todo algunos mostradores

aguantan bien la evaluación hay algunos mostradores hechos

en algunos centros públicos y en algunos hospitales es cierto inclusive cuando hay trozos de mostrador bajo

a las personas con movilidad reducida en silla de ruedas a veces como viene a plantear el informe del ararteko

yo creo que esta sensibilidad por los mostradores de accesos especialmente para las personas

es esencial los derechos individuales y sociales son de todos o de todas o no son y tienes deficiencias importantes es importante que

proposición no de ley de la compañera laura garrido que apoyamos elkarrekin podemos y luego planteamos algunos asuntos que tienen para acabar en nuestra opinión cierta importancia

más inclusiva como propone el ararteko y necesitamos preparar la sociedad de nuestro futuro porque nos toca a todos una cosa es que el treinta y ocho por ciento de la población tenga problemas de accesibilidad temporal o definitiva

problemas quiero decir de movilidad reducida o disfunciones de otro tipo pero las tasas de envejecimiento

aconsejan arreglar estos problemas cuanto antes porque nos van a tocar y

estos escenarios más inclusivos donde ya el consejero de salud aquí presente se ha comprometido públicamente a establecer planes de accesibilidad

se escuche a los colectivos afectados se escuche a los profesionales

a las personas cuidadoras que tienen bastante que decir de modo que los diagnósticos de situación y los planes de accesibilidad tengan que ver con opiniones también cuantitativas y cualitativas nada más solamente

la parlamentaria laura pues hombre que es bastante incomprensible lo que el partido nacionalista vasco y el partido

es el mismo informe del ararteko y donde no planteamos otra cosa que se cumpla la ley

muy difícil de entender que no haya consenso si no hay consenso en este parlamento en temas sencillos en temas de poca dimensión política

la accesibilidad a los centros sanitarios el diagnóstico está hecho la ley está hecha los colectivos han expresado sus opiniones todos los grupos políticos pensamos parecido

con los cinco grupos parlamentarios consensuando un asunto me consta que la parlamentaria del partido popular ha hecho un esfuerzo como la parlamentaria de bildu como nosotros mismo por qué el pnv y el psoe no firman

pertsonen artean para nosotras sirve de poco acometer ciertas obras concretas en algunos hospitales y creer que con eso ya se ha cumplido si no cambiamos de mentalidad porque para cumplir con unas condiciones mínimas de accesibilidad hay que pesar de manera trasversal y eso es generalmente lo que no se hace

que hay que construir centros públicos hospitales en este caso y adaptarlos a ese colectivo que tiene dificultades para acceder con normalidad

desde el inicio tenemos que pensar que todos y todas partimos en igualdad de condiciones aunque cada una de nosotras funcione de manera diversa con capacidades

o sin ella con un audífono o sin él con un bastón o sin él pero todas al mismo nivel porque si no se caerá en una política

que se aleja mucho de lo que hoy este grupo quiere plantear en esta cámara por eso hablábamos de esa necesidad de cambio de mentalidad urgente

por ejemplo en la mayoría de los hospitales dónde se sitúan las habitaciones

en la misma planta de verdad creen que pacientes con diferentes edades patologías y necesidades tienen que ubicarse en una misma planta solo porque necesiten un baño adaptado o una cama diferente por qué se les ubica en la misma planta teniendo en cuenta su manera de funcionar

por especialidad como a todo el mundo está claro que hay que empezar a pensar de otra manera zergatik egokituta dauden logelak

pongámonos en la piel de una persona sorda dentro de una resonancia

cualquiera que se haya hecho una resonancia magnética conoce perfectamente cómo es ese aparato pues nos sentiríamos completamente aisladas

con nosotras o al revés cómo lo haríamos y cómo nos enteraríamos

que es nuestro turno a una prueba si resulta que nos llaman por un altavoz cómo una persona

de que tiene que pasar una consulta cuando en algunas salas de espera solamente corre el número con un sonido baina

solicitamos que se elabore una estrategia con un diagnóstico previo que se tomen medidas urgentes

con los que nos encontramos y contando cómo no con los colectivos implicados que tienen mucho mucho que decir en este tema

cronograma consignación presupuestaria porque creemos que así es como se deben de hacer las cosas proponemos que se elabore un plan específico en cada osi

las matizaciones que también propone el ararteko y que se cumpla la ley de accesibilidad cómo no que lleva veinte años

en muchos aspectos dentro de esta enmienda transaccional se recogen aspectos claves como los que acabamos de señalar que eh bildu también proponía en su enmienda a la totalidad seguramente no es el acuerdo que podríamos haber firmado en un principio pero bueno es un acuerdo pensado para aprobarse por unanimidad en esta cámara es un acuerdo que recoge las cuestiones de accesibilidad mucho más allá de las físicas

por osi es un acuerdo que tiene en cuenta a las personas sordas a las persona ciegas a otro tipo de capacidades que

había dejado en algún aspecto sin atender y como decía seguramente no es el acuerdo que nos hubiera gustado como decía la señora garrido sí nos hemos dejado muchos pelos en la gatera pero nos parece un buen acuerdo y un acuerdo pensado para aprobar por unanimidad en esta cámara hori da

efectivamente el tema de la accesibilidad es un tema que no es nuevo

las dos últimas veces hasta este mismo martes había sido a raíz de ese informe elaborado por el ararteko y en el pasado pleno de control a una pregunta al consejero arriola que aunque no era en lo referente a osakidetza sí planteaba el cumplimiento de la ley en términos generales afectaba al departamento que el mismo dirige el cuatro de diciembre como ya se ha dicho aquí y como se ha repetido en innumerables ocasiones se cumplirán veinte años de la aprobación de la ley que pretendía en su planteamiento ir más allá de la eliminación de obstáculos

la ley de accesibilidad defiende como decía el señor arriola el otro día

e igualdad de todas las personas es cierto que aunque la ley está vigente y se han realizado

donde también se ha llevado este tema todavía es justo reconocer que queda mucho por hacer y ese es el caso que nos ocupa hoy y que nos trae la señora garrido

un informe cuyo objetivo era conocer y analizar la situación en el ámbito de la accesibilidad de los centros hospitalarios de euskadi para propiciar que las personas

pero no solo se refería a quienes tienen problemas en el acceso

y de ahí la importancia del acceso para las personas sordas y ciegas

a la que han de enfrentarse estas personas y que le piden a la administración para el cumplimiento de la ley en ese informe se planteaban dos cuestiones desde una base entendemos que objetiva adoptar las medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa

y pretendían o decían pretender concienciar a la administración sanitaria de la necesidad de cumplir la legislación vigente sobre accesibilidad tanto en el acceso como

con una fijación cronológica adecuado en los diferentes centros hospitalarios donde se recojan los problemas existentes con el fin de poder

los socialistas vascos en voz de mi compañera gloria sánchez ya dijimos en ese momento que para nosotros la dificultad estaba en una vez elaborados los planes

el determinar los recursos financieros para acometer las mejoras necesarias para eliminar todas las barreras que se hayan detectado en el mismo porque es verdad que el informe del ararteko de una forma detallada iba diciendo uno a uno posibles actuaciones pero también es verdad

hay que tener en cuenta cuáles son las posibilidades económicas de las que dispone en este caso el departamento del señor

no afecta a un único departamento ni hay un único responsable sino que toca a todas las consejerías

este asunto con eficiencia pero hace apenas cuarenta y ocho horas en la comparecencia de presupuestos el consejero de salud de este gobierno informó de la existencia de una partida presupuestaria

para la accesibilidad física y sensorial él mismo reconoció que no va a ser una cuantía suficiente para paliar todas las carencias a día de hoy porque hay que reconocer que tenemos muy buenos hospitales muy buenas infraestructuras pero efectivamente algunos tienen muchos años y sería complicado que un millón de euros

ojalá hubiéramos sido capaces de llegar a un acuerdo ojalá por unanimidad y en el que todos reconociéramos creo que todos reconocemos la necesidad de actuar en el tema de la accesibilidad

lo importante que fue esa ley que va a cumplir veinte años y la importancia que tiene el cumplimiento de la misma y ojalá hubiéramos llegado a un acuerdo

no vamos a votar esta enmienda que han suscrito tres grupos de la oposición pero sí me tuviera que quedar con algo me quedaría con

eso en el departamento del señor darpón y además hay una partida presupuestaria

y que también va dirigida al tema de la accesibilidad por lo tanto cuando se dice que la ley no se cumple es cierto queda mucho por hacer pero también es justo reconocer que el informe habla detalladamente de muchas actuaciones pero que también cuando a un

que se adjunte para poder cumplir lo que ese informe dice es justo reconocer que todo lo que se planteaba en ese informe que yo no digo que no sea cierto que por supuesto es cierto porque está hecho detalladamente es muy complicado que el departamento en este caso del señor darpón pueda cumplir con cada una de las peticiones que en él se hacía hay un millón de euros es el comienzo de un trabajo el reconocimiento de que hay un trabajo por hacer y como digo en este caso no ha sido posible la unanimidad pero seguiremos trabajando porque la accesibilidad ahonde en la libertad de aquellas personas que más lo necesitan nada más muchas gracias

permítame señora berasaluze que dude de los compromisos de este gobierno en materia de accesibilidad cuando este gobierno hoy

ha sido incapaz de avanzar y de mejorar un tema en el que claramente se han constatado carencias y deficiencias en un informe exhaustivo lo hemos alabado extraordinaria del ararteko sobre esta cuestión desde luego consideramos desde el grupo popular que hoy este gobierno claramente se ha tapado los ojos y los oídos ante un problema

y representante del partido nacionalista vasco me tendrá que explicar o tendrá que explicar al conjunto de la ciudadanía vasca por qué el gobierno

en el que encima hace dos días el señor consejero se comprometió a avanzar con un millón de euros en los presupuestos que es una cantidad insuficiente por qué ustedes hoy se niegan a firmar un acuerdo y a subscribir un acuerdo

espero que ustedes se abstengan en este acuerdo porque si no es para que todo el grupo nacionalista vasco cuando salga de este pleno y el gobierno se ponga más que rojo porque desde luego no tiene ninguna credibilidad ni ninguna coherencia política

de sus problemas que el eje de actuación de este gobierno son las personas y en un tema en el que han sido

se niegue a firmar un acuerdo dígame dónde está el problema cuando usted mismo ha hablado de estrategia hemos además añadido el término estrategia corporativa integral

las incoherencias del partido nacionalista vasco una vez más en este tema

hablamos de un periodo mucho más largo del que inicialmente recogía la iniciativa hablamos del primer periodo de sesiones de dos mil dieciocho es decir nos vamos a junio

elabore una estrategia el otro día y está aquí el señor consejero hablaba de una estrategia señor consejero dónde está el problema para que ustedes elaboren esa estrategia corporativa integral hasta junio que les damos de plazo en esta cámara

que la generosidad ha sido más que evidente hablamos de que a esta estrategia a petición también de lo que ustedes nos

lo hemos incorporado no sé dónde está el problema bueno parece ser que el problema estaba en el diagnóstico

cuando ya se parte de una estrategia de un diagnóstico que tiene

extraordinario por lo tanto no entendemos dónde está el problema el problema en la consignación presupuestaria cuando ustedes ya en este presupuesto han consignado

simplemente les pedimos que en esa estrategia planifiquen un cronograma de actuaciones con la habilitación presupuestaria correspondiente

no se quede este tema en flor de un día y no simplemente para quedar bien y sabiendo que había un informe del ararteko encima de la mesa y una iniciativa del partido popular

un millón de euros en los presupuestos que ya veremos si ejecutan y luego esto no tenga una continuidad en el resto de la legislatura por lo tanto no sabemos dónde está el problema en definitiva lamentamos que ustedes no subscriban este acuerdo ya digo que esperemos que por lo menos se abstengan y que posibiliten que al final salga aprobado

acuerdo que permite avanzar en una materia enormemente sensible donde hay carencias

no he sacado esta vez el informe pero el informe es un informe exhaustivo es de una institución que yo creo que tiene

un informe que no le podemos dejar como si no se hubiera realizado dicho informe como si no valiera para nada

esperemos señores del partido nacionalista vasco específicamente que ustedes se retraten

en este ámbito concreto de la accesibilidad a las infraestructuras hospitalarias

muy en duda ese compromiso de este gobierno con las personas eskerrik asko garrido andrea elkarrekin podemos uria jauna

eskerrik asko berriro tengo curiosidad por saber lo que va a votar el partido nacionalista vasco a esta enmienda transaccional tengo curiosidad por saber si va a votar en contra de una enmienda

enmienda acordada y preparada para registrar señora berasaluze

yo no sé algo me he debido de perder porque en el discurso usted habla de ciertas cuestiones que luego no plasman en ningún sitio

de la participación pero es que dónde plasman eso dónde porque si no apoyan esta enmienda transaccional desde luego en su enmienda no aparece

entonces no recogen ningún compromiso por escrito aquí se pueden decir muchas cosas pero firme firme o apoye no y además esta enmienda con la que se han quedado ustedes pues se quedan

no quieren diagnóstico diagnóstico previo no quieren hacer una planificación osi por osi

tiene necesidades propias y específicas hay hospitales que son relativamente nuevos hay hospitales que tienen muchos años cada osi tendrá sus necesidades y por eso es tan importante esa planificación específica no quieren hacer cronograma

no quieren consignar partidas presupuestarias en base a ese cronograma dónde está todo lo que

que en ningún sitio aparece reflejado huyen de la colaboración de los agentes sociales que trabajan en el ámbito de la diversidad funcional y para nosotras

porque le hemos oído de su boca decir que con que haya una intérprete de lengua de signos en un centro hospitalario se acaban

eso es conocer muy poco la realidad o las necesidades de ellos y de ellas eso es conocer muy poco hay que escucharles permitir que en unos presupuestos año

como prótesis o vehículos para inválidos ya sé que lo va a corregir señor consejero

demuestra también que tienen mucho que escuchar a esos colectivos son tan importantes los pequeños detalles

y eso dice mucho de dónde están ustedes lo único que quiere el partido nacionalista vasco en este caso es ir a lo fácil a una propuesta

basada en un lavado de cara en consignar uno millón de euros en un departamento y no sabemos cuánto en el otro no moverse de ahí y hacer cuatro o cinco

una enmienda transaccional asumible realizable urgente y acordada hasta hace una hora la tienen en sus manos tenemos

creemos que el tema lo merece tienen esa opción o pueden votar en contra de algo que usted también

aproximación a un acuerdo por supuesto que hemos tenido pero también hemos tenido una aproximación a un acuerdo usted y yo no esta mañana ayer por la noche quizá es usted la que tiene que dar explicaciones incluso en su grupo

eso para empezar en una negociación siempre hay al menos dos partes

y además para qué presentó usted esta pnl si está absolutamente de acuerdo con todo lo que el señor darpón vino a decir en la comisión del otro día la estrategia que usted propone

la consignación presupuestaria que usted pide también está y ahora van a tener ustedes la posibilidad además de presentar todas las propuestas y enmiendas que consideren oportunas en favor de la accesibilidad de la que tanto hablan

que me traten aquí y yo además señora blanco no dije en ningún caso lo que usted ha dicho de los intérpretes de los signos y demás

que ese servicio existe y que desde la asociación de las personas afectadas se valoraba positivamente lo que no quiere decir que no se tenga que mejorar pero no ponga en mi boca palabras cosas que yo no he dicho

enmiendas porque realmente creo que se podía haber llegado a otro acuerdo si usted quiere comprometer a este gobierno y a este departamento de salud

tiene adquirido y va a seguir adquiriendo podría usted haber llegado a un acuerdo conmigo y con la señora rojo y hubiese conseguido

salido adelante que creo que usted tenía hoy bastantes ganas de protagonismo y pocas ganas de llegar a un acuerdo eskerrik asko eskerrik asko berasaluze andrea

eitb el papel de e i te be ha sido fundamental durante los últimos treinta años para el desarrollo de la información la cultura vasca y el sector

a mil personas hoy no responde a las expectativas depositadas en ella y con retraso normativo que actualice su lugar

en los que es mejorable desde una profundización y actualización de sus misiones de servicio público la promoción del euskera con especial acento

y su presencia en e te be dos mayor implicación con el sector audiovisual propio y una atención especial

y a la cultura la posibilidad de trabajar con colectivos creativos y educativos para generar contenidos de nuevo tipo ampliaría su diversidad

que a nuestro entender se mantienen últimamente a la baja e i te be está ante su gran oportunidad para adaptar misiones y estructura a la era digital situar la digitalización

oportunidad que como un riesgo y configurarse como

andrea egun on guztioi voy a ser breve pero directa sobre la propuesta que nos ocupa hoy y nuestra aportación a la misma lo primero que hay que decir es que nos parece bien

necesaria y es una obligación que la dirección de e i te be evalúe su plan estratégico dos mil trece dos mil dieciséis nos sorprende que tengamos que venir a esta cámara a pedírselo y que no lo haya hecho ya en segundo lugar quiero decir que nosotras tenemos serias dudas

que no es otro que el cumplimiento de la función de servicio público función de servicio público recogida en la ley de creación del ente

en esta cámara ahora queda la espera de que los trabajos de la ponencia sigan su curso y de que el compromiso adquirido aquí se cumpla sobre el nuestro que no se tenga ninguna duda vamos a trabajar hasta el final para que esto vaya adelante

en otras ocasiones y a propósito de otras iniciativas hoy seguimos diciendo que a nuestro entender e i te be no está cumpliendo de forma adecuada su misión de servicio público y que por tanto no cumple con lo que establece la ley de creación del ente ni el contrato programa

muchas veces en esta cámara y no quisiera aburrirles algunas están muy contentas con el actual modelo pese a lo que les comento nosotras

volviendo al plan estratégico que nos ocupa hay que decir que según entendemos en elkarrekin podemos solo ratifica el fracaso de la gestión de la actual dirección encabezada por su directora general también se lo hemos dicho a ella cuando ha tenido la gentiliza de comparecer en la comisión de control de e i te be un fracaso que

un éxito de negocio poco más diré a este respecto todas las que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando

además de la evaluación del último plan estratégico que estaría muy bien se realizará con perspectiva de género solicitamos

un nuevo plan para el periodo dos mil diecinueve dos mil treinta esperamos que en este de una vez por todas se trabaje por ejemplo el objetivo transversal

la sobre representación masculina en todos los espacios y esta además sea un ejemplo de televisión pública participativa inclusiva paritaria e igualitaria de nuevo nos sorprende el hecho de que haya que solicitar que se elabore un nuevo plan y que no esté entre las obligaciones de la dirección presentarlo probablemente porque no compartimos el modelo de gobernanza en el que proponemos para e i te be que la dirección cuente con un proyecto que sea evaluado de forma continua en base a indicadores objetivables

definidos es por eso que hemos querido añadir que este plan estratégico que ahora se solicita incluya el enfoque de la reforma integral del ente que estamos abordando desde la ponencia por tanto nos parece positivo que haya un plan estratégico cuanto antes tal y como hemos comentado ya

que esté en relación con los trabajos orientaciones de la ponencia no entenderíamos que la dirección de e i te be siga trabajando en un marco ajeno a la reforma del ente ni que se

que hasta que esa reforma no llegue no va a hacer ningún cambio es obvio que aunque a nosotras no nos guste es esta dirección la que tiene que ir sentando las bases para el cambio del modelo de e i te be y que tiene que hacerlo desde ahora mismo porque va muy tarde porque cada vez va a peor y no sabemos muy bien
si son capaces ni tan siquiera de llevarlo adelante eskerrik asko eskerrik asko arana andrea

era antigua es verdad que después de esta iniciativa se ha acordado en esta cámara la creación de la ponencia de esa reforma integral de e i te be

porque como ha dicho el proponente la revolución tecnológica los nuevos modelos de televisión

o exigen revisar el modelo de etb

no compartamos la visión pero yo creo que sí compartimos el objetivo de que etb tiene que volver a ser una televisión pública

los vascos y de todas las vascas y hay cuestiones que se tienen que recoger en ese plan estratégico y que no pueden esperar a la finalización de esa ponencia

no solo a los grupos presentes en esta cámara debieran de preocupar y mucho al gobierno vasco porque no compartimos y no entendemos sobre todo la postura del gobierno vasco y concretamente el consejero de política lingüística la que expresó ayer en el debate de los presupuestos

a propuestas de algunos grupos dijo que no tenía que decir nada de cómo funcionaba e i te be

tiene que decir mucho que decir sobre e i te be porque aporta mucho dinero a e i te be a través del contrato programa de hecho del

para este dos mil dieciocho ciento veintitrés millónes cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos cincuenta y dos euros es decir el noventa coma dos por ciento del presupuesto el gobierno vasco y lo aporta porque tiene un contrato programa firmado con e i te be que le obliga a e i te be el cumplimiento de una serie de obligaciones que no vemos

en su momento a e i te be la promoción de nuestro idioma por ello debiera de darse más importancia

las audiencias que tiene e te be uno hemos hablado aquí del modelo pero creo que por encima del modelo está

una televisión pagada con el dinero de todos los vascos y de todas las vascas y que debiera de respetar la pluralidad de una sociedad como la nuestra pero no es así en absoluto no hay ningún respeto a la pluralidad y diversidad de pensamiento que convive en nuestra sociedad y que en este mismo parlamento está representada etb es en este momento

pero en modo alguno es el reflejo de la pluralidad de nuestra sociedad cuando eso debiera de ser su principal obligación debiera de ser nuestra televisión de aquí la que emite la información de aquí la que refleja la cultura de aquí el deporte de aquí debiera diferenciarse del resto de las cadenas televisivas

lo he dicho en muchas ocasiones debiera de ser una televisión temática entendiendo por temática y por su tema lo que importa en euskadi

sino con las televisiones locales entendiendo por local toda euskadi pero no lo hace como digo compite con las privadas y por ello tenemos

el trece por ciento y había medios en los que aunque aparecían criticando estas audiencias mañana tarde

el nueve por ciento aunque ha habido momentos del siete por ciento por ejemplo el miércoles uno de noviembre su audiencia fue siete coma dos por ciento y en e te be uno lo decía

a duras penas cuando debiera de ser la joya de e i te be y en este momento es el patito feo de e i te be por ejemplo el martes fue el uno coma tres y en este momento es verdad que hay mayores audiencias el otro día leyendo

se preguntaba si el procés catalán era el mejor reality de la televisión en la actualidad

decía que desde luego para e i te be sí porque no conseguía una audiencias

del procés catalán desde el conquistador del fin del mundo y muchas veces se nos ha dicho desde el ente público que las audiencias no son lo más importante que hay programas que se tienen que emitir por el carácter de servicio público que tiene el ente y nosotros podemos estar de acuerdo

pero por eso nos resulta paradójico que precisamente fueron los índices de audiencia uno de los argumentos esgrimidos en el consejo de administración por parte de la directora cuando

por parte de este grupo le preguntamos por el tratamiento que cuantitativamente y cualitativamente ha tenido el procés catalán cuantitativamente ha sido un despropósito ha habido días de nueve y diez horas

ha distado mucho que desear se ha dado una imagen romántica una imagen idílica se ha

se ha mostrado con profusión las imágenes de aquellos que estaban a favor

las imágenes de aquellos que quieren que cataluña siga siendo españa y europa

no presenta contenidos de actualidad que permitan al ciudadano crear su propia opinión cada informativo cada programa de actualidad deja clara que etb

para dirigir la opinión de los vascos y de las vascas hacia las posiciones nacionalistas y esta manipulación es perfectamente constatable en la propia elección de las noticias y en su tratamiento los contenidos políticos pesan por encima de todos los demás y ello es que claramente se puede ver en las cuatro horas diarias que se dedica a política frente por ejemplo las treinta que se dedica

son los contenidos políticos los que permiten de manera

políticos y por lo tanto son los que están en la cabeza de los responsables de etb a la hora de hacer la programación y por ello es una programación

y decía yo que el gobierno vasco tiene mucho que decir me pregunto si el gobierno vasco se planteará si cumple o no cumple la obligación de etb

y a lo mejor la respuesta la da el hecho de que creo que el gobierno vasco cree que sí lo cumple entiende

la de estar al servicio del gobierno porque etb hoy además es un instrumento político al servicio del gobierno el principal objetivo que tienen es hacer de altavoz de la estrategia política del nacionalismo gobernante y reforzar única y exclusivamente los mensajes que van en esa

del nacionalismo sube a categoría de noticia lo que no se queda siempre en la trastienda y ofrecen así una actualidad sesgada e interesada

vasca todo el mundo ve a los intereses que sirve y por eso cada vez se despega más de nuestra televisión lanza siempre el mensaje político el que conviene e interesa al nacionalismo es algo

para muchos ciudadanos ya ven claramente que etb es la televisión del partido nacionalista vasco por eso

que es necesario un cambio en etb necesario un plan estratégico para saber qué camino seguir para saber qué proyecto adoptar pero sobretodo también es necesario

que profesionalice etb es necesario un cambio que suponga un apoyo a los profesionales y no como se decía aquí a las productoras siempre las mismas y siempre del mismo corte un cambio que suponga una profesionalización de la televisión pública dirigirse hacia unos objetivos distintos y con una mentalidad diferente un cambio en el que se premie la capacitación profesional y no el amiguismo político un cambio que dé entrada a criterios profesionales en el consejo de administración

audiovisuales una televisión pública capaz de presentar una programación que refleje

le importa y que sea capaz de ofrecer respuestas del nacionalismo una televisión pública en definitiva en la que todos y todas las vascas nos podamos ver representados en este momento etb

señora presidenta buenos días a todas a todos empezaremos por destacar esos grandes profesionales y quiero empezar acordándome de ana

con uno de los premios del periodismo vasco dos mil diecisiete además por su gran labor en las zonas de conflicto lo que

una de las mejores enseñas de presentación y debería serlo aquí en euskadi fuera de aquí además es mujer señora arana o sea las profesionales buenas y de calidad existen en e i te be es uno de los objetivos

esa carrera profesional que debe darle su sitio a las personas que trabajan en dicha entidad

lo ha hecho bien por eso junto al resto de premiados pero ella es de e i te be quería felicitarla estamos debatiendo muchas cuestiones

y en él se fija una serie de objetivos y sobre esos objetivos y la valoración del anterior plan estratégico pues puede haber efectivamente sus valoraciones

que hay otras cuestiones otros objetivos que deben de ser evaluados

antes de plantear los cambios y es lo que figuraba en la enmienda que presentamos

y que además hemos consensuado ahora todos los grupos que aunque parezca que no hemos llegado

en cuanto a esos objetivos y sobre todo la necesidad y yo quiero subrayarlo de hacer una evaluación del cumplimento efectivamente de esos objetivos del plan

ahora bien dicho eso el grupo socialista cree que asumida la necesidad de la reforma integral en la que ya estamos trabajando estamos en un periodo de interinidad

creemos que lo está la actual dirección como lo está también el actual consejo de administración porque como ya hemos dicho una de las cosas que queremos cambiar

en ese sentido lo resalto esto no quiere decir ni mucho menos que esté anulada la función de control que corresponde a este parlamento y tampoco quiere decir que la actual dirección

del cumplimiento de sus objetivos o de explicar o no explicar cómo lo consigue de que los grupos

por eso a los socialistas a las socialistas que tenemos un empeño

nos parecería oportuno que la directora compareciera para explicar el desarrollo y cumplimiento de este plan estratégico por supuesto

hiciera las adaptaciones que tengan que hacer al plan y además

o interviniera sobre los trabajos de la ponencia porque es muy interesante que sepa

en el marco y la metodología que se están realizando y los cambios que pueden de esos trabajos que se están haciendo una medida de rendición de cuentas insisto y lo vuelvo a repetir en un periodo de provisionalidad que a mí grupo le preocupa que e i te be e i te be no le debería de sorprender a nadie yo creo que somos uno de los que presentó hace dos años un modelo equivocado con las variaciones o aportaciones que se le quieran hacer desde otros grupos pero tenemos nuestro modelo que vamos a intentar proponer contrastar

sacar alguna cuestión también después de los trabajos de la ponencia pero como somos el único grupo que en el debate de política general a través

y puso encima de la mesa como uno de los principales objetivos para nosotros en esta legislatura es la reforma integral de e i te be

no yo no me siento cómoda porque yo tengo una propuesta

para nuestra televisión insisto que no podrá ser el del partido socialista porque deberá ser consensuado con todas y con todos por eso le digo

pues nosotros también estamos muy atentos a la ponencia estamos un poco preocupados porque nos hemos ralentizado en el inicio pero estamos comprometidos y lo conoce usted que estamos comprometidos que esa reforma intente cumplir

previstos y que hemos consensuado entre todas y todos yo creo que vamos avanzando bien porque se han dado pasos importantes incluso entre la metodología por lo que auguro que el debate de las medidas de reforma de la legislación aplicable será interesante pero cada vez lo veo más próximo ahora se trata

de afrontarlo por lo tanto es un compromiso que tenemos con los electores las electoras que nos votaron porque lo hemos destacado siempre que era uno de nuestros objetivos es un compromiso expreso incluido en el acuerdo de gobierno también la reforma integral de e i te be y nos hemos puesto recogiendo las opiniones de diversos expertos escuchando al resto de grupos incluso en los órganos del parlamento y fuera de ellos

la radio y televisión pública vasca el objetivo tiene que ser que sea de todos y de todas la dignificación y el reconocimiento de todas las vascas como servicio público ese es el objetivo que tiene que realizar este parlamento y las personas a las que nos han encomendado el trabajo y los grupos para hacerlo y en eso seguramente unos y otras tenemos que dejar muchos pelos en la gatera que se dice

no se trata de imponer sino que se trata de escuchar más cuando es una cuestión que interesa interesa a toda la ciudadanía vasca

ni ideológica tan importante es que ese servicio público sirva para los que estamos aquí sentados aquí sentadas como para la ciudadanía que nos escucha cuanto mayor reconocimiento al menos

para esa ciudadanía que yo creo que todas queremos mejor informada y mejor formada el partido socialista insisto desde hace dos años

recabar incluso a través de esta propuesta la información respecto a la ponencia de la dirección

la reforma integral de e i te be cambiará muchas de las cosas de los planes estratégicos y muchas muchos lo sabemos muchas gracias eskerrik asko romero

que está terminado y que pedimos por unanimidad pediremos hoy

desde el dos mil trece hasta el dos mil dieciséis por tanto espero que cumpla ese requerimiento que le hacemos desde aquí

la valoración pero yéndome a la introducción de ese plan estratégico que veremos su evaluación en menos de mes y medio decía el propio plan estratégico que se aprobó en el consejo de administración en el que también tiene mucho que ver esta cámara decía que fija la hoja de ruta para el periodo de dos mil trece dos mil dieciséis que es un plan abierto que han participado en las reflexión estratégica más de doscientos profesionales entre profesionales de etb y profesionales externos que representan los stakeholders de la sociedad vasca y que

quieren repensar el futuro y quieren construirlo el equipo directivo y el equipo de profesionales de e i te be necesitan ser agentes de ese cambio necesitan estar dentro de los cambios necesarios porque es evidente y yo creo que todos reconocemos que tenemos que trabajar para posicionar

frente a los retos de futuro que son difíciles no solamente para e i te be sino para todos los medios

pero ellos afirman también en el propio plan estratégico que e i te be se ha constituido en una referencia fundamental en el conjunto de euskal herria y que cuenta con un importante

que había que hacer que teníamos que utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance como puede ser el sociometro

para poder cambiar las cosas pues tenemos que medirlas evaluarlas y para eso tenemos hecha la ponencia y yo espero

que vayamos dando pasos firmes hacía esa nueva etb que todos queremos los puntos en los que estamos

en la ponencia para la reforma integral de etb son los retos

de la alfabetización mediática de la innovación de los contenidos culturales en fin creo que tenemos muchísimo trabajo sé también que estamos poniendo en marcha en esa ponencia se están esta la presidenta está trabajando agradezco los trabajos

desde la propia ponencia para poder tener ese espacio abierto para trabajar

y yo creo que tenemos que respetar los dos planos tenemos dos planos uno que es el de la reforma integral del ente de la radio televisión pública de nuestro servicio público

todos los días e i te be levanta la persiana todos los días tiene que poner en el aire no sé cuántas horas no sé cuantos minutos de emisión creo que hay que reconocer el esfuerzo que hace todos los profesionales y todas las profesionales del ente y ese trabajo del día a día también debe de acompasarse

a los profesionales a los y las profesionales que están haciendo el trabajo estratégico a largo plazo los retos son importantes

pero el día a día también hay que cubrirlo y hay que dejar trabajar a los que lo llevan a cabo eskerrik asko

muy brevemente hay que dejar trabajar evidentemente y es verdad que tenemos esa ponencia en la que

en esta sesión de hoy pero una cosa no quita la otra

y es necesario hacer una serie de valoraciones que yo creo que son urgentes usted decía

yo creo que debiera de analizar muy mucho la dirección de e i te be si

debiera ser la joya de nuestra televisión si tiene

en una sociedad que cada vez vive más en euskera yo creo que de verdad es para planteárselo y para no esperar al resultado de la ponencia sino para tomar medidas en ese plan estratégico desde ya nada más y reiterar que vamos a apoyar la enmienda transaccional

ondo dago bai eskerrik asko sí señora llanos yo no niego que haya que trabajar día a día por eso lo he dicho y por eso lo he puesto de manifiesto pero

de que el plan estratégico y el contrato programa deben ir acompasados tanto los principios de servicios públicos como los indicadores de sostenibilidad que se fijan

acompasarse con la ponencia a eso me refería en cualquier caso por eso hemos pedido la evaluación del plan estratégico lo vamos a

antes de fin de año también pedimos unas líneas estratégicas en el segundo punto de la transacción hemos pedido que

lo que le vaya viniendo de la ponencia también yo creo que tenemos que trabajar a la par y esa colaboración necesaria por tanto yo agradecer

a todos y a todas a que trabajemos mucho en la ponencia eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea